el parlamento vasco invita a la ciudadanía a adoptar compromisos personales

asimismo insta a las instituciones que tenemos una responsabilidad crucial en su erradicación

para lograr su definitiva desaparición de tal modo que no se vuelva a producir ningún acto de violencia contra las mujeres y mucho menos asesinatos como el que ha costado la vida

la sociedad vasca hay prioridades pero

indar politikoen arteko akordio politikoetan no podemos calificarlo de otra manera se vende y se vende además muy barato desde que la señora idoia mendia

todos y todas ya sabíamos qué poco recorrido iba a tener ese teatrillo ese burdo intento por subir un poco su ya devaluado precio ha resultado realmente patético eso sí

porque van a reformar sus dos campos de fútbol felicidades también a los vecinos de barakaldo

las obras de la variante nuestra enhorabuena nuestra más sincera enhorabuena a los de ribera baja por su piscina

felicidades a los de eibar por las mejoras en el espacio cultural errebal cómo no felicidades también a los vecinos de irun por sus festejos del centenario del real unión

estas y algunas más son las mejoras sociales quince millónes de los treinta y cinco

elige su propia política de acuerdos para seguir dando vueltas entre las cuatro paredes del acuario del marco jurídico político agotado sigan comprando

para llevar a este pueblo a un mar de soberanía lleno de riesgos pero también de oportunidades

sean los únicos dueños de su futuro político económico y social traten de llegar a acuerdos con eh bildu les anticipo una tarea más

pero con resultados a buen seguro más gratificantes para el conjunto de habitantes del país este mismo parlamento

puede ser un acuario donde dar vueltas sin parar entre cuatro cristales o puede ser la chalupa que nos lleve a mar abierto los y las independentistas ya sabemos lo que queremos sabemos a dónde queremos ir y continuamos abiertos a acuerdos de país atea ixtera nentorrela esan dut

berdin idazten dute inviable la posibilidad de seguir recurriendo a la vía del endeudamiento como fuente de financiación adicional berdina

las consecuencias derivadas de la falta de soberanía económica gogoeta bat da que restringe aunar las posibilidades de articular una política presupuestaria acorde con las necesidades de nuestro territorio las exigencias de estabilidad presupuestaria impuestas desde el estado español o el cobro de unos mayores importantes por el concepto de cupo

pero asume como limitación controlar el endeudamiento

el importe de la deuda que se amortiza ni más ni menos estamos hablando que se acude a un nuevo endeudamiento de sesenta y uno coma setenta millónes sesenta y dos millónes básicamente y amortizará la deuda que tiene

elabora una ley saco y me explico se ha limitado a recopilar toda la normativa existente para la lucha contra la pobreza es decir esta ley viene a mantener la situación existente hasta el momento

la pobreza existente arrazoitzen du kontrako botoa noviembre del dos mil esta era una época interesante políticamente desgraciadamente se rompió el escenario

entre la épica y la política pues la izquierda abertzale

abandonó el parlamento la situación impedía estar en el parlamento cuando se discutió y se aprobó la ley contra la exclusión social en diciembre del dos mil se aprueba la ley de carta de derechos sociales en el origen estaba también una iniciativa popular euskal herritarrok tampoco participó en la votación

en dos mil tres se vuelve a modificar la ley en esta ocasión la denominación

para pedir la devolución del proyecto de ley del gobierno en dos mil siete se modifica la ley doce barra noventa y ocho contra la exclusión social y la ley

en el parlamento en ese momento y el partido popular son los únicos que votan en contra

y la del dos mil de carta de derechos sociales

la izquierda abertzale es el único grupo que se abstiene en diciembre del dos mil

de garantía de ingresos y para la inclusión social con el voto en contra de la izquierda abertzale mantiene hasta el pleno la enmienda de totalidad y hace

el título se aprueba pero la ley no en dos mil once se modifica la ley

ocho la izquierda abertzale está fuera del parlamento con la ilegalización

pero sin embargo aralar y eusko alkartasuna en ese momento votan en contra lo que quiero decir es que en definitiva

nunca ha votado a favor ni de la ley contra la exclusión social

de garantía de ingresos nunca mientras desde el consenso más o menos mayoritario se ha ido construyendo

porque las exigencias o la compatibilidad de distintas luchas estaban fuera de este parlamento entonces cuando menos sería bueno que a ese ciudadano de vitoria que ha venido con sobre se le pudiera recordar cuál ha sido la trayectoria

sobre este punto afortunadamente de los noes y de las ausencias hubo una tímida abstención y hace un mes hace un mes

que estaba aplicando y practicando el partido popular tres formaciones políticas

bildu y partido socialista hemos refrendado

baina joan gaitezen el famoso impuesto de grandes fortunas

no hay que despreciar que patrimonio de grandes fortunas sea el uno por ciento de la recaudación

por supuesto cuidar pero yo no sé si ha sido una equivocación pero es evidente que lo que hasta

los bienes afectos a una actividad económica o empresarial no estaban

del setenta y cinco por ciento se paga el veinticinco eso es así pero da la casualidad que

que el taller el de la pequeña empresa amigo o no querido o no el pabellón y la maquina

que era una inversión en la empresa en este momento pasa a ser patrimonio y tiene que tributar por ello pasa que lo hace con una bonificación del sesenta y cinco por ciento curiosamente la gente

no tiene esa vinculación empresarial paga menos ese es el resultado

pero ha sucedido porque alguien ya nos está sugiriendo que habría que presentar alguna enmienda

que quienes menos pagan precisamente son los que más tienen porque no tienen afectada la actividad empresarial porque el marginal

porque pagaría en gipuzkoa porque es el territorio donde menos pagaría ahora todos los que tienen ligada

pagan más que en otros territorios hori hala da

estamos siete puntos por debajo es verdad de la media europea

también articular acuerdos para que esa fiscalidad sobre la que tenemos una capacidad de gestión pues también redunde